el martes tuvimos la oportunidad en comisión de hablar largo y tendido de este tema pensábamos que se había resuelto ya la postura de cada grupo

hay que decir que desde los años ochenta el sector lechero europeo ha sido regulado desde bruselas a través de las cuotas lácteas

y la previsible caída de los precios y se estableció las llamadas cuotas nacionales de producción

la demanda y la producción lo que ustedes llamaban ahora soberanía alimentaria es muy antiguo

cuota que se repartía entre los ganadores de cada estado miembro y que estaban obligados a cumplir y quien incumplía por exceso y vendía era severamente multado en españa se aceptó una cuota muy inferior a la que debía de tener porque los ganadores ocultaron la producción real

pues siempre con esos miedos creían que así podían evitar impuestos etcétera

siempre tuvimos una cuota muy inferior a la demanda de los consumidores si se consumía de media

como consecuencia francia y otros estados miembros suministraban a esta parte del mercado español

productos lácteos esta situación generó momentos críticos para el sector

el año dos mil siete creo recordar fue el año que mayor precio tuvo la leche y a principios del año dos mil ocho españa

se pidió un aumento de cuota pensando ingenuamente que solo se aumentaría a españa pero el aumento de cuota fue para todos los estados miembros de manera lineal un dos por ciento con lo cual hicimos un pan con unas tortas

esta cuota hasta el año dos mil quince que se eliminaron las cuotas podíamos decir que fueron unos linces pero esa es la realidad

hoy en europa hay más oferta que demanda ha coincidido el aumento de cuota

los precios han bajado y los costes de producción superan el precio por litro que recibían los ganaderos el sector de leche el sector lácteo en el país vasco representa

hablamos de ciento sesenta y cinco millónes de kilos anuales que en términos económicos supone sesenta y cinco millónes de euros

que comercializan leche en el país vasco el señor lazarobaster nos enseñaba una gráfica pero es que en el año dos mil quince el ritmo de entrega de leche es un cinco por ciento superior al año dos mil catorce por lo tanto el volumen

de productores ni con el número de vacas porque si la eficiencia ganadera es más elevada pues el número de vacas nos dice poco

que se produce por lo tanto hoy podemos decir en el dos mil quince que tenemos un cinco por ciento más de entrega esa es la realidad son los datos son datos objetivos mire yo

en los años sesenta el modelo era distinto en todas las casas había vacas de ganado de leche y de producción lechera había cereal había porcino

las explotaciones por lo tanto el número no implica nada implica la producción y la producción podemos decir que en el dos mil quince es más alta que en el dos mil catorce

a poner en valor lo que es uno y otro y efectivamente nos de otra realidad

no sé cuál es mejor no por lo tanto si estamos produciendo ciento sesenta y cinco millónes de litros y consumimos ciento ochenta tenemos que producir más para llegar a lo que estamos consumiendo por lo tanto

es así y la eliminación de las cuotas nos ha afectado en menor grado eso es una realidad objetiva o sea eso es así quiere decir esto

claro que sí aun así como le decía tenemos debilidades que se deben de corregir tenemos una dependencia excesiva de la entrega de líquido a la industria un noventa y siete coma cinco por ciento de lo que producimos se entrega directamente a la industria se pueden hacer cosas claro que sí lo hemos dicho no

pero había otros intereses había que apoyar otras cosas o proteger otras producciones y por lo tanto esto ni tocar no

de leche de vaca que ha salido ha sido boicoteado desde la administración desde sectores desde etcétera pero ha sido boicoteado y todos conocemos

proyectos de transformación que han tenido que cerrar por agotamiento

presentarse en ferias por lo tanto no hemos hecho las cosas bien y estamos pues a remolque y tenemos aquí una oferta de quesos de leche de vaca de otras zonas donde yo los sábados si voy al mercado de vitoria

que no puede ser del país vasco porque es que no hacemos por lo tanto hay demanda y no hacemos oferta esa es una de las circunstancias y una de la debilidad que tenemos no nos hablaba de la carga ganadera por hectárea alta en gipuzkoa probablemente

habrá habido momentos que ha sido más alta la carga ganadera y usted lo que dice es que tiene que aumentar por lo tanto va a poner más carga ganadera no yo le he interpretado eso en sus palabras compramos el pienso fuera claro a usted le parece bien que se produzca colza aquí la colza que da rendimiento

usted se contradice es que ustedes mismos ponen pegas por lo tanto

línea lógica y coherente con lo que predican

es que si tenemos que bajar el precio del pienso

intentar que el sector le siga nosotros hemos hecho una enmienda y hemos llegado a una enmienda de transacción con el resto de los grupos y nuestras ideas van primero

el cooperativismo del sector lácteo porque eso nos ha demostrado que es bueno que ha hecho que nuestro sector lechero soporte mejor este envite de la eliminación de cuotas y además es bueno porque se pueden fortalecer a la hora de

porque aumenta el volumen de la producción a negociar y eso refuerza la fortaleza del sector lácteo también décimos que hay que desarrollar los canales cortos de la transformación que no es la panacea

explotaciones de los lácteos transformando ahora

pero no nos parece mal que de una vez por todas la administración también

todo el sector porque tiene cada uno su línea de competencias y creemos que es importante lo que el sector opine en esto y además

el mantenimiento del sector lácteo en la comunidad autónoma creemos que es imprescindible necesario y que tiene unos valores que nos aporta y que no podemos dejar que eso se caiga de alguna manera o se debilite por lo tanto yo creo que la enmienda que hemos acordado es bastante

nos debemos de centrar en lo importante y creo que las líneas que hemos marcado en esta enmienda de transacción son

pues probablemente pero primero vamos a fortalecer el sector lácteo de nuestra comunidad autónoma
y darle herramientas para que pueda soportar mejor los envites del mercado que indudablemente los va a tener nada más muchas gracias eskerrik asko

buenas tardes a todos señorías realmente eh bildu nos ha traído una propuesta que podemos compartir en su filosofía

en una propuesta práctica para resolver el problema que hoy tienen los productores porque también compartimos la preocupación del proponente

el fin de la cuota láctea en efecto provoca la caída de los precios de la leche y un futuro sin cuotas lácteas

por eso es necesario poner en marcha medidas para amortiguar el impacto negativo del fin de las cuotas lácteas que ha marcado

los precios de la leche son los de hace veinte años son por tanto unos precios de ruina y de una ruina de los precios podemos ir a ir a la ruina de los ganaderos y de la ruina de los ganaderos podemos y nos va a llevar a la ruina de las explotaciones

a la ruina de todo el sector de cientos y cientos de explotaciones que nosotros queremos proteger y que

los productores están indefensos frente a la gran industria láctea estas grandes empresas pueden pagar aproximadamente

por litro cuando este litro cuesta producirlo

pequeños productores están haciendo un esfuerzo en unirse a empresas cooperativas están consiguiendo mantener una dignidad en el precio y por tanto están consiguiendo defender la dignidad del trabajo que realizan

si no se interviene el mercado terminará arrastrando a todos los socialistas vascos apostamos por estas intervenciones porque creemos

para la vertebración del medio rural nosotros queremos un país vertebrado cohesionado en todos sus ámbitos en lo social

reforzar el papel del sector primario del mundo rural y de la potencialidad que sigue ofreciendo a pesar de la globalización frente a esta defensa que ya hemos reiterado de forma mayoritaria en este parlamento

siguen sufriendo la pasividad la improvisación y la falta de iniciativas del gobierno central este gobierno que ya se despide no ha evitado lo que ha tenido en sus manos haber evitado

y por tanto no ha hecho lo que debía hacer debía y tenía colocado y realmente podía haber ayudado mucho más al sector al sector que ahora realmente puede desaparecer y corre el riesgo sobre todo de pequeñas y medianas explotaciones el gobierno de españa

para acabar con estas cuotas que han regulado el mercado más de treinta años gracias a estas cuotas evitado las sobre producciones que pudieran hundir los precios de la leche y con ellos

ganadero el objetivo inicial de la cuota introducida en mil novecientos ochenta y cuatro era limitar el gasto público de la unión europea

y los ingresos de los productores también pretendían ayudar a mantener la actividad de las zonas más desfavorecidas y menos comprometidas

entendemos que un futuro sin cuotas lácteas erosiona aún más el poder negociador de los ganaderos

aquí la mera queja no nos sirve no vale esto es lo que hay esta es la herencia que nos deja un gobierno central al sector lácteo la pregunta es si podemos hacer algo aquí sí aquí con nuestras competencias para demostrar que de verdad estamos al lado del sector

por eso proponemos implementar un plan extraordinario de apoyo al sector lácteo lo que planteamos y algo que nos parece fundamental

vinculados con el desarrollo de canales cortos y transformación dotar de ayudas definidas en la estructuración transformación y comercialización que pueda incidir directamente en el futuro del sector

para que los productores se organicen con bases cooperativistas sólidas y bien dimensionadas que se han mostrado eficientes eficaces y frente a las grandes industrias

programas de ayuda destinados a los grupos de productores y cooperación que sirvan para desarrollar nuevos productos que puedan incidir directamente

que la leche deja de ser producto de enganche a los precios inferiores del coste y que introduzca el concepto de precio justo de compra a los productores todo esto supone implicar en este esfuerzo a los departamentos de competitividad consumo empleo y nos agrada saber que el partido que apoya al gobierno comparte esta visión

por eso defendemos este acuerdo realista y práctico y que además a nuestras instituciones apela la responsabilidad de los consumidores y de las cadenas de alimentación por eso es necesario poner en marcha medidas para poder ayudar y afrontar el impacto negativo

lo que marca la unión europea desde nuestro grupo socialista nuestro compromiso con el sector lácteo y pensamos que los esfuerzos compartidos suelen tener éxito hoy y para el futuro de todo el sector

que nos apoye la enmienda yo creo que es una enmienda completa que recoge muy bien en qué forma se puede ayudar al sector qué ayudas podemos reforzar y yo creo que es importante la propuesta que usted hacía no está mal

y luego ya hablaremos de etiquetas de otra forma de transformar de otra forma de ayudar al sector pero yo creo que es muy importante que hoy por unanimidad votemos y vea el sector que está respaldado por esta institución
nada más y muchas gracias eskerrik asko fresno andrea

mahaiburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on guztioi sé que la hora no es la mejor el tema no es apasionante pero en cualquier caso el tema

económicamente pesa poco pero que es enormemente relevante y su ausencia la echaríamos en falta y a veces nos jugamos

en esta misma sala nos concitó y con los mismos protagonistas de hoy el sector ovino el de la leche poco antes nos había concitado también el de vacuno el de la leche y el que tenía cuotas hoy nos reúne otra vez el vacuno

digamos que el paquete del pnl de la leche sector en cualquier caso en permanente crisis y ejemplo de que la ue nos está sirviendo para bien poco

quizás por eso me duela especialmente que la unión entre países europeos cuyo objetivo durante muchos años ha sido la política agrícola común siga

errando permanentemente no puede ser que después de tantos años de intentar diferentes políticas para poner en marcha la de cuotas

la ue la elimine para provocar lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir ya con meses de antelación seguramente el sistema de cuotas no era perfecto en tanto primaba unos frente a otros al tiempo que provocaba

vendiendo una cuota que había recibido gratis de la administración pero así todo el sistema de cuotas lograba equilibrar lo más complejo de equilibrar en la agricultura

parecía pues que si el sistema de cuotas lograba aunque fuese a duras penas un cierto equilibrio de precios y una cierta justicia en el pago al productor de un justiprecio lo más lógico hubiera sido mantenerlo

y llegar a lo que todo el mundo avisó que iba a venir y llegó también es cierto

tampoco ha ocurrido tanto tiempo como para que se llene la campiña europea

de vacas en producción como para derrumbar tan de repente los precios lo que parece indicar que hay otro responsable directo de esta crisis más allá de la unión europea y que ha logrado acelerarla y que no es otro que la gran distribución independientemente de que la crisis se haya desatado en agosto entre otras cosas porque en verano tradicionalmente desciende el consumo de la leche y por tanto su precio algunas industrias y algunos distribuidores de leche

y pagarles con importantes descuentos y por debajo del costo de producción para de esa manera y sabiendo utilizar el bajo precio de la leche como atractivo en los lineales

se le añade la contención en el consumo y que la producción está dispersa y con escaso poder de negociación

lo que obliga a una comercialización extra en el mercado interior porque lo que no vendemos allá lo tenemos que vender aquí tenemos la tormenta perfecta pero en este caso de leche este panorama tan inquietante en europa gracias a dios en euskadi

parece que viene afectándonos menos de las cuatrocientos treinta y seis explotaciones de leche en euskadi que comercializan ciento sesenta y cinco millónes de kilos como ya se ha dicho

podemos afirmar que la situación de crisis real afecta exactamente a dieciocho explotaciones

dieciocho explotaciones ha sido de cero coma dos euros por kilo en el resto del sector vasco ha sido diez veces menos de dos céntimos de euros por kilo

y están en lo cierto pero yo también seguiré en lo mío y a los números me remito y ante la posible pregunta de cuál es la razón

optimismo que lógicamente se harán quienes desconozcan este sector que seguro que los hay

si no fuera por la voluntad histórica de unión de tantos ganaderos de áraba bizkaia y gipuzkoa si no fuera por la voluntad expresa

y aquí no puedo olvidarme de citar expresamente al que más trabajó en ese tema que fue el ex consejero de agricultura ya fallecido

si no fuera por ellos hoy no tendríamos en euskadi sector lechero

el funcionamiento sectorial en base a un cooperativismo fuerte no solo con capacidad de negociación

y por tanto de la capacidad de recogida de leche en todos los rincones hoy estaríamos lamentándonos de lo no hecho

de hecho las dieciocho explotaciones detectadas en crisis han venido funcionando con

hasta la caída del precio generalizado la cual sí ha podido ser soportada

a la vez socia mayoritaria de iparlat una vez desatada la tormenta tanto la ue como el propio gobierno español y por supuesto el gobierno vasco se han puesto con las manos a la obras para intentar abordar con urgencia el caos generado

ni las medidas que el ministerio tiene intención de poner en marcha porque no forman parte de nuestro negociado y además porque así de inicio poco confiamos en ella visto que ni el gobierno español fue capaz de parar por falta de convicción la eliminación del sistema

qué confianza podemos tener en quienes por acción u omisión eliminaron un sistema

y qué confianza podemos tener en quienes ante los múltiples avisos de lo que iba a ocurrir y acabó ocurriendo

y hoy se ven abocados a tomar decisiones improvisadas con carácter de urgencia por eso la transacción que hemos firmado intenta trasladar al gobierno vasco

para seguir apuntalando un sector que seguimos necesitando

básicamente el trabajo que le pedimos al gobierno se basa en tres ejes que ya se han citado aquí

y convertir en cómplice a la distribución el cooperativismo activo y fuerte es la clave para sostener el sector lácteo capaz de aguantar las tormentas de la leche

estimulando la integración en el sistema de todos los productores por otro lado la dependencia de la mayoría del sector lácteo de la leche líquida en exclusiva es una dependencia excesivamente arriesgada más cuando es un producto primario

y diferenciados productos por ello se le pide al gobierno que dinamice las ayudas

para favorecer proyectos e inversiones que diversifiquen la producción y así

y el tercer bloque se refiere a la necesidad imperiosa de abordar la problemática que genera la gran distribución a través de bajadas significativas de precios

ese beneficio que puede obtener el supermercado siempre es perjuicio para el ganadero y pone en riesgo

la administración el gobierno vasco debe mediar entre ambas partes y debe presionar al sector de la distribución

costo de la producción la cooperación y la persecución del fraude son en este caso las dos caras de una misma moneda

todas ellas medidas ya analizadas y si no puestas en marcha todas en puestas de ser ejecutadas lo que viene a concluir

con lo que este parlamento sugiere o que este parlamento ha entendido que las medidas que va a poner en marcha el gobierno

se están tomando en contexto con todo el sector en el sentido más amplio

que se propondrán medidas para prevenir la crisis del sector lácteo porque hay que intervenir que lo peor

que por si no lo saben el azar tiene en general muy mala leche

en cualquier caso es que la previsión de estructurar un sector de conformar cooperativas y de aunar producción con transformación y comercialización

a la desaprensión de cierta distribución y a la incapacidad de un madrileño ministerio porque como dijo séneca cuando se está en medio de la adversidad ya es tarde para ser cauto y digo yo

algunos datos equivocados y además por puntualizar cuando habla de que el gobierno de españa no ha hecho los deberes yo le voy a recordar lo que decía

cuestionó que el reparto de la cuota láctea se estima en dos mil quince

no del pp desde luego tal y como ha asegurado la comisión pero exigió un incremento de la cantidad a recibir por españa para que si finalmente se acaba

sean competitivas en el ámbito de todo el continente

qué hizo el gobierno de españa en el dos mil ocho pedir un aumento de cuota quería solo para españa pero la comisión le dijo un dos por ciento lineal con lo cual se elevó la cuota europea un dos por ciento

toneladas de aumento pero mire lo que pasó entonces fue que

gobierno socialista no hizo absolutamente nada para

se eliminasen en el dos mil quince entre otras cosas porque acudían muy poco a bruselas y cuando acudían

de igual manera pidieron la eliminación de los derechos de plantación del viñedo y ahí tenemos la eliminación de los derecho de plantación de viñedo en el dos mil doce cuando entra el nuevo gobierno

dejaron todos los planes hidrológicos sin aprobar estaban las multas de bruselas por la inacción de su gobierno y resulta

por lo tanto cuando hable del gobierno de españa especifique de qué gobierno habla porque si aquí hay algún culpable y responsable es el gobierno que en el dos mil ocho

hicieron todo lo contrario de lo que había que hacer solamente porque

cuestión propagandística y electoralista dar más cuota a galicia con lo cual hoy tienen el problema que tienen en galicia gracias a su trabajo

creo que en estos cuatro años que ha estado gobernando el señor rajoy y el pp creo que tienen suficientemente responsabilidad

en la unión europea realmente era su responsabilidad y no han actuado no han hecho nada han sido mudos

a la unión europea para que ocurra todo este problema que tenemos ahora con las cuotas realmente el partido socialista en bruselas ha trabajado

a todas estas tramitaciones que veían que podía ser un fracaso y un peligro para la desaparición del sector y realmente desde el partido socialista en madrid también ha presentado

iniciativas ha trabajado y ha dejado mucho tiempo y se ha esforzado por protestar por ver

realmente también ha quedado suficientemente claro que el sector lácteo vasco busca su supervivencia reduciendo el noventa por ciento de la dependencia de la leche

debe adoptar y reforzar medidas de apoyo para paralizar la situación del sector en euskadi con el fin de valorar la situación en el sector

trabajar conjuntamente con las diputaciones forales así como los principales agentes sectoriales organizaciones agrarias centros de gestión y asociaciones sectoriales cooperativas compradores de leche

transformadora y la gran distribución la evaluación del sector productivo lácteo podríamos remarcarla en dos puntos a destacar la necesidad de una fuerte reestructuración y la pérdida significativa de las explotaciones y reses en poco más de diez años se han perdido un importante porcentaje tanto en las explotaciones que existen como en la cabaña ganadera

entre las razones más importantes destacaríamos cuatro globalización el producto tiende a moverse a zonas más favorables geográficamente

con medidas orientadas a razones económicas costes de producción

cercanía o núcleo de consumo transformación y políticas concentración y organizaciones en los últimos eslabones de la cadena de valoración

detrimento de la gran atomización y falta de estructuración del sector productor incidiendo negativamente en su poder negociador desaparición limitación de los instrumentos de la regulación del mercado previstos en la pac

exógenas cierre del mercado ruso intereses generales

por lo tanto debemos reconocer que las explotaciones más pequeñas con menos de

y que concentran el doce coma cinco por ciento de la producción pueden verse afectadas negativamente llegando a la desaparición de muchas de ellas

a partir del treinta y uno de marzo no vale ya nada

ya que el dinero invertido en cuota no ha permitido hacer otras cosas el nuevo escenario que como futuro va a tener los ganaderos es muy incierto

cuándo se produce a qué precio con qué parámetros de calidad y las zonas de recogida

es una leche más barata no nos podemos olvidar de todas las explotaciones denominadas como zona de montaña

y desfavorecidas al considerar que estas tendrán isiltasuna mesedez escasa

y de la eliminación de las cuotas realmente quisiéramos comentar

de ayudas de lo que debe hacer aquí el gobierno vasco para reforzar las explotaciones agrarias debería fomentar la formación y asesoramiento apoyo a inversiones en explotaciones

creación de agrupaciones de productores ayuda a la cooperación canales cortos y comercialización ayuda a zonas desfavorecidas ayudar

y apoyo a las inversiones e instalaciones el sector debe contar y se debe reforzar

en su futuro y ya por último me gustaría decir que quiero finalizar diciendo que el grupo socialista seguirá trabajando apoyando y ayudando con un compromiso de trabajo con y para el sector lácteo

porque queremos que remonte porque hay que trabajar para que remonte y mejore su situación

tan tediosa no obstante ha venido aderezada porque

el pp y el partido socialista está hb que está en campaña y entonces

y luego sí me hombre mi discurso es superficial gracias por el calificativo ahora usted es el calificador del discurso de los demás ya me dirá cuando es sakona cuando cree que

porque decir por ejemplo

y la culpa es del gobierno o que

o incluso la señora lópez de ocariz ha dicho que se han cortocircuitado todos los intentos de procesos de transformación de leche sino me dan ejemplos

casuísticas eso no es superficial eso es frívolo es frívolo díganme los casos explíquenlos porque el gobierno vasco

tradicionalmente subvencionaba siempre los proyectos de transformación de leche

se cuentan cuatro generalidades y se le acusa al señor del pnv de superficial y usted de una profundidad extraordinaria porque claro

del descenso masivo de explotaciones que es cierto y es preocupante no obstante yo aquí había venido

sobre la situación creada por la liberalización del sector lácteo es decir la desaparición de cuotas un añadido a los problemas pero no el sector de la leche es mucho más conflictivo que las ayudas que puedan dar el gobierno no piense en este país en su orografía en la realidad de lo que está ocurriendo en el sector lácteo en europa en la presión que genera la industria y los puestos de trabajo que genera la industria y usted valóreme si a lo mejor

los que siguen aguantando con el sector de la leche realmente porque si usted cree que se va a solucionar el sector lácteo o su liberalización con su programa

no sé con leche ecológica con circuitos cortos son ayudas son

en el contexto en el que nos movemos señor lazarobaster no lo soluciona para nada

y además le voy a decir me dice que con el gobierno vasco ha descendido no sé cuánto la leche y las explotaciones y es cierto la curva esa es una realidad objetiva y tenemos responsabilidad supongo que mucha gente

pero es que las diputaciones forales también tienen su responsabilidad en sus planes de ayuda también a las explotaciones lecheras y mire un dato que

dos mil once dos mil catorce periodo de las últimas diputaciones forales desaparición de explotaciones ganaderas de leche en álava trece por ciento y en guipúzcoa veinticinco por ciento

o gobernaba bildu y su sakona pues eso entonces es más le voy a decir le voy a decir más

por el sistema que las instituciones sí presionaron mucho de estructurar un sector de crear una cooperativa fuerte

hoy hoy con la desaparición de las cuotas lácteas hoy hubiera desaparecido

gracias señora presidenta buenas tardes a todos espero no extenderme mucho porque además que dada la hora y el pleno

pues no es muy de recibo y además porque el propósito de esta iniciativa es bien concreto aunque supongo que después en las intervenciones de los grupos

para hacer todo tipo de críticas y casi sin ejercer de pitonisa que últimamente se me da bastante bien seguro seguro que se van a meter con el gobierno

porque es verdad que en precampaña estamos todos no sé si es que el partido nacionalista vasco no se va a presentar

pero en fin de los primeros debates que se sustanciaron en esta cámara fue precisamente el relativo a la paga extra de los funcionarios se presentó un proyecto de ley relativo a medidas sobre la paga extra de los funcionarios y se ufanaba el consejero

de su gobierno en la presentación de este primer proyecto de ley la verdad es que el trabajo debió de ser arduo debió de ser costoso

al borde del agotamiento y al borde de la extenuación porque la verdad es que muchas

pero en fin extenuaciones aparte como decía aquel proyecto de ley tenía por objeto según rezaba el mismo dar solución a la situación creada por real decreto ley de trece de julio de dos mil doce de medidas extraordinarias

y la resolución adoptada por el tribunal constitucional acordando la suspensión de la decisión adoptada por el ejecutivo socialista de hacer efectiva la paga extra a los empleados públicos correspondiente en diciembre

ese real decreto ley de trece de julio de dos mil doce establecía efectivamente la suspensión que no la supresión el aplazamiento de la paga extraordinaria de ese año la medida claramente se dijo entonces insisto

el pago de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de dos mil doce fue una medida difícil

gustado tener que tomar créanme al gobierno del partido popular no le gustó tenerla que tomar pero fue obligada por la grave situación económica que se atravesaba en ese momento

era necesario rebajar el gasto público y contribuir a la reducción del déficit el gobierno

el aplazamiento de la paga de diciembre de dos mil doce algunos en ese momento se rasgaron las vestiduras e incluso recurrieron la decisión

sin embargo esos mismos que entonces se rasgaron las vestiduras años antes se mantuvieron en silencio y miraron para otro lado cuando el gobierno

redujo un cinco por ciento las retribuciones de los funcionarios una medida de carácter permanente que les supuso a los mismos una pérdida del poder adquisitivo que no se ha recuperado

por los gobiernos de las comunidades autónomas del partido popular aquí en euskadi no sucedió lo mismo aquí el gobierno vasco como digo en manos socialistas todavía

pose como puro postureo porque sabía de antemano cuál iba a ser el resultado de esa impugnación constituía por tanto además de una actitud desleal una actitud irresponsable porque todos conocían que la legislación básica del estado es de obligado cumplimiento por lo que su actitud como digo generaba una gran inseguridad jurídica y una gran confusión en un tema tan sensible como este

como decía antes la situación económica de aquel verano dos mil doce era grave fue el momento más difícil para la economía española

porque eso es lo que traía la confianza y la estabilidad la situación era tan grave que el propio señor lehendakari habló de emergencia nacional

no resuelve las cosas sino que las empeora hay que estar a la altura de las circunstancias y ciertamente algunos no lo estuvieron

que permitiesen mejorar la economía y lo que hizo el gobierno del partido popular fue eso aunque esas medidas fueran como digo impopulares pero esas medidas son las que ha permitido que hoy hoy en este momento

una quimera sino que empiece a verse como una realidad aunque quede todavía y hay que reconocerlo y todos lo reconocemos muchas cosas por hacer pues bien como digo

se dijo que la paga extra se iba a devolver se llegó a un compromiso con los trabajadores públicos y con sus representantes sindicales y ese compromiso se está cumpliendo este mismo año se ha devuelto el veinticinco por ciento a los funcionarios dependientes de la administración del estado a principios de este año y el once de septiembre

aprobó el real decreto ley para la devolución del veintiséis coma cuatro por ciento de la paga extra a los funcionarios de la administración general del estado que la han cobrado en el mes de octubre

y asimismo también se ha comprometido que en el año dos mil dieciséis cobrarán el cincuenta por ciento restante

y ha establecido una consignación presupuestaria para eso y ello como digo ha sido posible por la mejora de la economía

hacer frente a estos desembolsos gracias a que ha habido un aumento de la recaudación y en el año dos mil trece por parte del gobierno vasco

lo antes posible para que el personal vasco pudiese recuperar la totalidad de la paga extra del año dos mil doce cuanto antes por lo tanto vista esta petición

hacer más devoluciones de la paga extra suspendida se procedería hacerlo de inmediato el gobierno vasco

de veinte millónes de euros y es más hay que recordar aquí

el señor erkoreka puso de manifiesto que aumentaría un uno por ciento al sueldo de los funcionarios

de esa paga extra suspendida en diciembre de dos mil doce si el gobierno central hacía lo mismo

y se desbloqueaban los impedimentos legales para que ambas cosas se pudiesen realizar se iban a realizar

esos impedimentos han desaparecido ahora existe la posibilidad de hacer otra devolución porque como décimos así lo permite la legislación del estado

de ese veinticinco por ciento y así lo han hecho también otras administraciones públicas como por ejemplo la diputación foral de álava que ha procedido a su devolución y que ha podido hacerlo porque tenían una consignación económica para ello sin embargo en el caso del gobierno vasco no sabemos si esta consignación existe o no

es que no se va a hacer porque ya se ha dicho que no se va a hacer que la situación financiera no lo permite expresamente el señor erkoreka señaló que si la diputación de álava

a la paga extra pues bendita sea su situación financiera esas fueron sus palabras textuales bendita sea su situación financiera pero que este no era el caso del gobierno vasco que no podía hacer frente a este pago ni en septiembre ni en octubre

y la pregunta es por qué sabiendo que se iba a tener que devolver porque como digo era un aplazamiento por qué pidiendo la resolución desde el gobierno vasco del recurso cuanto antes para poder proceder a la devolución por qué

ahora no se hace el señor erkoreka señaló que la situación económica como digo del gobierno vasco no lo permite pero lo que habría que preguntar es qué ha hecho o qué no ha hecho el gobierno vasco para que su situación económica

porque era previsible que esto se tuviera que hacer en el dos mil quince con lo cual creemos que debieran de haberse cuadrado las cuentas

y ver de dónde se podían obtener esos recursos para pagar a los funcionarios porque los funcionarios se merecían este compromiso no es de recibo que se critique pero luego que cuando se tenga que actuar no se actúe y no se devuelva ese veinticinco por ciento que le corresponde a los funcionarios

el primero de la fila el primero de la pancarta siempre y si tiene ya que

ni digamos pero sin embargo para gobernar para actuar para abonar para tomar medidas que puedan

que han tenido que hacer muchos sacrificios en esta crisis económica que han aportado mucho para la mejora de la economía sin mermar la calidad del servicio público para eso el gobierno vasco la verdad es que no se compromete

y en caso de respuesta insatisfactoria haber planteado una moción pero realmente

es que esta cámara le instase al gobierno a realizar ese pago y la interpelación y la moción era un plazo demasiado largo por eso hemos presentado esta proposición no de ley

porque este real decreto no lo olvidemos permite

la devolución de la paga es decir que queda en manos de las autoridades autonómicas creemos por lo tanto que es una cuestión de voluntad política que si se quiere se puede proceder a la devolución de hecho la mesa de este parlamento ya ha acordado restituir un veinticinco por ciento de la paga extra a quienes le fue suprimido en el año dos mil doce

y lo que se puso de manifiesto es que el veinticinco por ciento se pagaría a principios del dos mil dieciséis pero el cincuenta por ciento restante

ni fecha ni consignación presupuestaria porque parece que lo que se ha consignado únicamente en presupuestos es el referido a ese segundo pago del veinticinco por ciento

al gobierno vasco es algo bien claro y bien sencillo es verdad que luego

pero lo que propone esta iniciativa es bien claro y bien sencillo

y que este gobierno se comprometa como otros ya lo han hecho a que a principios del dos mil dieciséis se devuelva el cincuenta por ciento restante la cuestión está si se quiere hacer o no si hay voluntad política de hacerlo o no la hay eso
es lo único que hay que decir nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen ordezkaria

gracias presidenta señorías los socialistas

como elemento nuclear de las condiciones en las que se garantizan sus derechos también sobre la forma de restituir una paga extraordinaria que fue

cuando un gobierno pone parches donde toca hablar de derechos puede pasar lo que ocurre ahora que se quede en esta materia detrás incluso

que el gobierno de rajoy que ya es difícil el gobierno de españa tenía

y ha pedido un crédito para intentar contentar a los empleados públicos pensando conseguir un mayor número de botos en las próximas elecciones generales

encima y su partido se ha lanzado a esa carrera y nos trae esa propuesta para destacar las bondades del ejecutivo que pasará a la historia por ser

en la historia de la democracia española sino por haberlo hecho de esta forma con la prepotencia de una mayoría absoluta que ha demostrado y que ha demostrado su incapacidad de entender en país en el que vive

sigan en el camino de rajoy y nosotros no estamos por la labor porque nosotros queremos dejar constancia de nuestro rechazo a la medidas impuestas por ese gobierno y que restituyan todos los derechos

también el que asiste a los empleados públicos a recuperar el sueldo establecido en las leyes presupuestarias y aunque el resultado sea parecido

opuesto con la supresión de aquella paga en el dos mil doce

y decidió imponer ese problema a los demás el gobierno socialista

en aquel momento intento cumplir con sus obligaciones de retribución y el gobierno de españa no les dejó en su día denunciamos aquella injusticia pero

nada más llegar a ajuria enea una ley que adelantaba las pagas extras anuladas en seis meses todos los grupos de la oposición nos abstuvimos

porque bastaba que aquellos empleados que pudiesen tener problema por no recibir

pudieran solicitar un adelanto de nómina y a esa ley que intentaba aliviar las consecuencias de decisiones políticas

laborales solo hacia referencia al adelanto de pagas así que en octubre los empleados públicos ya han cobrado esas extras de dos mil quince

podrán además recuperar parte de lo perdido hace tres años aquí no lo van a hacer la ley que se vendió como la compensación por una injusticia se ha vuelto injusta pero es que aquella ley fallaba en un gran pilar la negociación previa con los representantes de los trabajadores conocer

y como cita el proponente la diputación de álava a iniciativa de la diputación foral del área que

lo primero que hizo fue sentarse con los trabajadores para estudiar la fórmula de devolución

se devuelva el veinticinco por ciento y a principio del que viene el cincuenta por ciento que aún les quedaría pendientes lo que ha hecho el gobierno vasco por el contrario sentarles a los sindicatos tres días antes de aprobar el proyecto presupuestario para decirles que no le va a devolver esa cantidad al mismo ritmo que al resto es decir les ha informado de una decisión tomada

no ha negociado con ellos podrá alegar dificultades presupuestarias

va a incrementar los salarios en un uno por ciento pero lo que no podrá alegar es que no han dispuesto de tres años para poder cerrar algún acuerdo con los trabajadores

la falta de previsión de una transitoriedad no se determina el tiempo de aplicación ni la forma de restituir la cantidad perdida no solo obligaba a todos los empleados tuvieran o no urgencias domésticas a que en adelante cambiaban las fechas de devengo de su salarios este gobierno que tantas carencias ha mostrado

mostró en esta ley sus limitaciones los socialistas no sabemos

apresurada previsión es su responsabilidad ustedes gobiernan lo que sí queremos es que aprenda a sentarse en una mesa de diálogo

la forma en la que ir restituyendo todos los que se han ido dejando en esta crisis por eso defendemos nuestra enmienda transaccional la enmienda firmada por el grupo con el grupo eh bildu y el grupo socialista

denunciamos en el primer punto la aniquilación continuada de los servicios públicos y el continuo deterioro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras públicos por parte del gobierno de españa y proponemos en un segundo punto una forma de abono que se proceda

extra no abonada en el ejercicio dos mil doce antes del treinta y uno de diciembre del dos mil quince y el resto el cincuenta por ciento que quedaría pendiente todavía en el año dos mil dieciséis pero previa una negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras en el modo de efectuar

y por último también se insta al parlamento vasco a sí mismo a negociar con los sindicatos la recuperación

destruido durante estos años tomando como referencia el último acuerdo laboral

harrituta porque señora llanos usted

ha empezado diciendo que con mucha pompa o con mucha

que había que decir la verdad en dos mil doce y ahora hay que decir la verdad o no tienen que decir la verdad ustedes

qué dicen de las apreciaciones y de las consideraciones que en relaciona al presupuesto del dos mil quince y del dos mil dieciséis se han hecho desde la comisión europea

de supuesto ajuste que el gobierno siguiente probablemente tendrá que abordar

la verdad se dice dependiendo de las circunstancias y el contexto en el que cada uno está en el contexto en el que vivimos el gobierno

decía usted en relación al abono de la paga por qué si sabían que había que hacerlo el único que sabía

su equipo de campaña electoral que dio la orden al señor montoro para que esto se pudiera hacer

y sin tener en cuenta las dificultades que en otras instituciones podían generar esta decisión un acto

lo sabían rajoy y su equipo de campaña electoral insisto no es una cuestión de voluntad política dice usted la voluntad política del pnv y ha empezado manifestando claramente cual es la voluntad

las instituciones gobernadas por el partido nacionalista vasco pagaran la totalidad de la paga extra del dos mil doce en función

señora sánchez la injusta ley

de la paga extra pues mire no sé si usted sabrá que aquí esa que aquí en euskadi y en navarra son las únicas comunidades

según usted tan injusta ley para adelantar el pago de las pagas para que no tuviera incidencia la

en ninguna otra comunidad se ha tomado la misma decisión y ha sido una decisión que ha favorecido a los empleados públicos a los setenta mil empleados públicos del gobierno vasco y eso

pero es más no sé si se le ha olvidado que el presupuesto de este año del dos mil quince lo hemos aprobado conjuntamente no sé si debo recordárselo no son dificultades presupuestarias dice

no no son dificultades presupuestarias cómo pueden ustedes decir

nadie le permite que el objetivo del déficit establecido

como a ustedes un año les permitieron luego tuvieron un plan de reequilibrio económico financiero

las dificultades presupuestarias que otras instituciones públicas están viviendo no son dificultades así no me llama mucho la atención también señora llanos que usted diga que se tiene que abonar el veinticinco por ciento segundo que por cierto muchas comunidades autónomas gobernadas por ustedes y ustedes

ni siquiera el primer cuarto el partido popular y el partido socialista que tanto se les llena aquí la boca poniendo deberes donde ustedes gobiernan no lo hacen y lo harán y lo harán

en los textos que ha aprobado para permitir el pago del segundo cuarto y del cincuenta por ciento en todos en los dos tanto en el real decreto ley diez barra dos mil quince de once de septiembre al que usted alusión como también en los presupuestos del dos mil dieciséis se dice que se permitirá siempre y cuando de forma motivada señora llanos

se pueda manifestar que la situación económica financiera de la institución en cuestión lo permite no es voluntad política eso lo han escrito ustedes y sabe usted muy bien que de no cumplir con eso

y quien pueda sufrir será el gobierno o la institución correspondiente

usted señora sánchez tiene también un poco

porque usted se acuerda de una cumbre europea que se celebró

y se acuerda qué pasó después de esa cumbre europea quién gobernaba en dos mil diez en españa

zapatero anunció los recortes impuestos por la unión europea

la reducción del sueldo a los funcionarios los recortes de las pensiones

echando por tierra toda una política económica seguida hasta el momento

la ayuda del alquiler de la vivienda a los jóvenes los sucesivos

ustedes gobernaban y con el apoyo del partido popular

del objetivo del déficit sacralizando el cumplimiento del objetivo del déficit incluyéndolo en el artículo ciento treinta y cinco de la constitución española ustedes y todos los demás tenemos que cumplir y tienen el coraje

antes un compañero me decía señora llanos hablando de este debate de lo sorprendente de este debate que el partido popular sigue la estrategia del bombero pirómano primero enciende el fuego para luego venir a apagarlo

porque el pirómano pirómano es el pirómano no es bombero

popular nos proponen que instemos al gobierno vasco a pagar inmediatamente a los funcionarios el veinticinco por ciento

dos mil dieciséis voy a votar a favor de la iniciativa aunque me temo que nos faltarán votos suficientes para que esta iniciativa salga adelante ya en su momento nos opusimos al recorte a la supresión de la paga

o por el gobierno vasco recortes en educación recortes en sanidad recortes en gasto social recortes en pensiones

de todos estos recortes de todos estos recortes también los que señalaba la señora gorospe de todos los recortes impulsados por el gobierno vasco anterior

y también en contra de todos los recortes impulsados por este gobierno vasco del partido nacionalista vasco y también en contra de todos los recortes impulsados en su momento

siempre nos hemos posicionado en contra y aquí y en el conjunto de españa cuando han faltado o faltan recursos y ciertamente siempre faltan recursos

los llamen los gobiernos recortes los llamen ajustes o los llamen reducciones presupuestarias siempre nos hemos posicionado en contra y siempre hemos presentado

y hemos hablado efectivamente aquí y en el congreso de los diputados de la necesidad de reformar el modelo de estado y hemos hablado de la reforma del entramado institucional vasco

o la necesidad de suprimir o fusionar municipios hemos hablado del cierre de entes superfluos y chiringuitos varios que existen aquí y en el conjunto de españa y hemos hablado de la necesidad de eliminar las duplicidades y las ineficiencias que existen en el estado autonómico español y también las que

identitarias o superfluas y hemos abogado siempre por las inversiones productivas

o electoralistas que tanto dinero nos han costado en los últimos años y hemos hablado de impulsar también y hemos defendido reformas fiscales

y hemos planteado también impulsar medidas contra la corrupción saben ustedes cuánto cuesta la corrupción en españa

millónes de euros anuales según un estudio recientemente realizado por la universidad de las palmas

es ahí donde hay que intervenir donde este gobierno y especialmente el gobierno de españa tiene que intervenir también para impulsar medidas contra la corrupción esas sí que son medidas antipopulares pero populares del partido popular en el caso de los recortes y la supresión de sueldos a los funcionarios y empleados públicos siempre hemos dicho que es algo especialmente grave

indispensables para garantizar el estado del bienestar y satisfacer la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos hablamos de médicos hablamos de enfermeros

personal esencial para garantizar los servicios públicos y no es que hayan tenido que realizar grandes sacrificios sino que se han impulsado recortes injustos contra todos ellos habiendo podido impulsar otro tipo de medidas perfectamente posibles de llevar a cabo pero que

insistentemente se nieguen a impulsar por tanto del mismo modo que nos opusimos a los recortes y a la bajada del sueldo de los empleados públicos o su posposición en el tiempo defendemos que el gobierno vasco abone lo que tuvo que recortar efectivamente lo que tuvo que recortar en su momento porque recortó el gobierno de españa dicho esto evidentemente es un sarcasmo

debe a los funcionarios dado que fue el partido popular quien recortó en su momento del mismo modo que es un sarcasmo que el gobierno de españa decida pagar justo

que pagará en enero lo que suprimió antes es una estrategia claramente electoral

por no hablar de las mentiras presupuestarias evidenciadas y denunciadas por la propia comisión europea en fin es una vergüenza

en plena campaña electoral o en plena campaña preelectoral en todo caso nosotros llevamos desde dos mil doce exigiendo que se devuelva lo recortado por lo tanto votaremos a favor de la iniciativa dicho esto también cabe decir que la decisión del gobierno de españa es claramente insuficiente es un parche

consolidados y el estado de bienestar durante los últimos años ha sido laminado por lo tanto

insuficiente el señor erkoreka y el gobierno vasco dicen que la situación económica del gobierno no lo permite no permite devolver ya esas cantidades a los empleados públicos lo cual demuestra básicamente una cosa que el partido nacionalista vasco es muy mal gestor y que efectivamente

que euskadi necesita en todo caso ya digo que nosotros votaremos a favor de la iniciativa y esperamos que el gobierno vasco en caso de que salga

gracias de nuevo señora presidenta brevemente

por el apoyo a la iniciativa evidentemente siempre es un apoyo

porque como he dicho antes nunca es un momento malo para darle al gobierno de rajoy aunque haga bien las cosas o no las haga nunca es un momento malo se hablaba aquí de las mentiras presupuestarias

no decía la verdad y la decía cuando puso de manifiesto lo mal que estaba la situación económica cuando cogió el gobierno

y desde luego no es el gobierno de mariano rajoy sino los organismos internacionales

cuál ha sido el avance que la situación económica de españa ha tenido en estos años y no se trata de lavar la cara evidentemente todas las medidas

pues siempre son electoralistas da igual que elección siempre son electoralistas y si no se hace se crítica porque no se hace y no es cuestión de lavarse la cara ni de electoralismo

del momento económico en el que se ha podido hacer que es verdad que es necesario la devolución de otros derechos que también se están haciendo y que se tienen que seguir haciendo sí

estamos hablando como yo decía en mi primera intervención de esta al partido nacionalista vasco señora gorospe no se ponga tan trascendente yo comprendo que venir aquí a decir que la situación económica no lo permite

económicamente estamos peor que el gobierno de españa y económicamente estamos peor que la diputación de álava por ejemplo que sí ha podido pagar y que no estaba gestionada cuando propuso esta partida por el partido nacionalista vasco

nosotros es verdad que lo pone en el decreto si la situación económica lo permite pero ya vemos que después de tres años de gobierno nacionalista la situación económica

no permite pagar la paga a los funcionarios no lo permite luego menos flores

y los funcionarios ya ven y son los primeros paganos de que no estamos tan bien a ustedes les ha fallado una cosa porque siempre se agarran a la excusa verdad es que el gobierno central no me deja y ahora que les dejan claro es que

y están diciendo que no por qué porque estamos mal económicamente bien

pero yo creo que se pueden hacer ejercicios financieros para pagar

esa paga extra yo creo que sí es cuestión de voluntad

vascos les hubiera venido bien que esto también hubiera sido legislación básica ustedes hubieran tenido un motivo más de queja y de lamento de los martes de erkoreka

pues no lo van a recibir y con arreglo al partido socialista bueno aquí antes he hablado

pero total y absolutamente de verdad el señor zapatero vivía en los mundos de yupi y así dejó españa como la dejó y ustedes siguen viviendo en los mundos de yupi

porque que me digan que ahora no estamos mejor que hace cuatro años de verdad háganselo mirar háganselo mirar

y de verdad ustedes negociaron con los funcionarios la rebaja del cinco por ciento

vamos y aquí el gobierno de patxi lópez que luego contra el aplazamiento

en el cinco por ciento acataron sin rechistar

supongo que negociado con los sindicatos supongo pero sin rechistar y aquí yo me imagino en el primer punto que ustedes yo voy a pedir la votación por puntos porque no estoy de acuerdo con el primero a pesar de que yo creo

de la aniquilación continua de los servicios públicos y el deterioro de los derechos de los trabajadores del gobierno de españa fundamentalmente es de su gobierno fundamentalmente de su gobierno ahora me parece que

pero tanto como aniquilarlos ahora ustedes lo van a afirmar

en la negociación presupuestaria en la negociación presupuestaria metan una partida para que haya una consignación para pagar la paga extra

son el sostén de este gobierno eso sí no están de acuerdo con el ochenta y tantos por ciento de sus medidas pero aún así

y les aprueban los presupuestos pues en la negociación presupuestaria porque mire en los presupuestos de la diputación de álava que tenía previsto

digo yo que no tendrá línea directa que no lo sé pero previeron previeron

a esos presupuestos y en los de aquí en los de este año dos mil quince que no hay partida votaron que sí y en el dos mil dieciséis como le digo

van a volverlas a votar y sin esa partida muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eh bildu arrondo andrea zurea da hitza

bueno comienzo vamos a ver

como si fuera el partido popular la inmaculada concepción la culpa es siempre es de todos lo demás ustedes

como si ustedes fueran absolutamente diferentes y se olvida

el quitar o el suspender la paga extra en el año dos mil doce les supuso a los funcionarios una reducción por ciento de su salario y en su día dijeron decían ustedes es que es paga extra y es que la paga extra es salario es que yo recuerde que aquello se dijo

digo la paga extra es salario porque el salario se puede dividir por doce

salario un salario que tiene que recibir el trabajador pero dice no no nosotros solo la suspendimos ya la cobrarán es que ustedes han inventado un montón de conceptos jurídicos en estos años han inventado el despido en diferido

le quito el salario el mes que me da la gana a los trabajadores y se lo difiero y se lo pago cuando me da la gano es que ya los derechos de los trabajadores pues pueden desaparecer

han venido haciendo ustedes durante estos últimos cuatro años reconozcan sus errores ustedes quitaron el siete por ciento del salario de ese año a los funcionarios y además

recibir el siete por ciento menos de salario y durante estos cuatro años

un tanto por ciento cada año pero no han querido han seguido congelando durante cuatro años el salario con lo cual han seguido castigando

a los funcionarios entonces no vengan como que no la culpa la tiene todo lo que

un año y otro y otro han estado castigando a los funcionarios y durante estos años hemos vivido los peores recortes

laborales y me está hablando aquí de que no es que lo vamos a hacer porque ha mejorado la situación no

si es que está clarísimo ustedes lo hacen lo empezaron a pagar porque había una sentencia que les obligó porque lo recurrieron los sindicatos

es que se olvidan de que hay una sentencia que les dijo ustedes están obligados a empezar a tener que pagar eso y a partir de ahí empieza el

ustedes empiezan a pagar porque hay una sentencia que tienen que cumplir y a partir de ahí como estamos en proceso electoral dicen vamos a devolverlo todo deprisa y corriendo voy a pedir un crédito y así quedo bien y a ver si así

pero no me hable de la maravilla de situación que hay

en el mercado laboral maravillosa mucho mejor que la que

con contratos en precario con jóvenes que ya no son mileuristas que son cieneuristas vamos a ver
con una pobreza que hay isiltasuna mesedez isiltasuna como no había hace cuatro años qué me está contando usted

el mundo de yupi el suyo bueno por otro lado isiltasuna isiltasuna mesedez tranquilícenseme ustedes por otro lado

con la señora gorospe bueno nosotros tenemos un problema cuando se decide

primero tenemos que ver cómo se devuelve esas cantidades del dos mil doce pero también tenemos el problema de qué se hace al final con ese adelanto porque si no llegará un mes que los trabajadores se pueden los funcionarios se pueden quedar sin cobrar un mes entonces tendrá usted

con los representantes de los trabajadores y negociar esa situación porque no solamente estamos hablando de que hay un cincuenta por ciento que se queda sin pagar es que también hay una norma que adelantó eso y se está cobrando por adelantado entonces todo ese mejunje

y decidir cómo se resuelve de la mejor forma posible para que quede tal cual se negocie con ellos y eso es lo que le he dicho yo en mi intervención pero es que eso es lo lógico lo normal y lo que se ha venido haciendo y lo lógico que ustedes hablen con los representantes de los trabajadores

y eso es por donde va la enmienda transaccional y eso es lo que le pedimos desde aquí nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea

maneiro hablaba usted que el pnv es mal gestor mire el pnv

como la evidencia durante años y durante un montón de instituciones gestionadas lo manifiesta es buen gestor lo que no tenemos es la oportunidad de conocer cómo es upyd gestionando porque ustedes nunca han gestionado nada y claro desde el que

señora llanos la diputación de álava la diputación de gipuzkoa muchos ayuntamientos muchos han abonado en función de sus situación económico financiera no solo la diputación de álava y se pagará en el resto de instituciones también hablábamos de la verdad y se lo han recordado usted señora llanos pertenece a un grupo parlamentario que apoyó unos presupuestos en la legislatura anterior

lleva al gobierno actual a destinar de doscientos noventa y cuatro millónes de incremento

de amortización previsto y esos presupuestos los aprobaron ustedes el nivel de endeudamiento del gobierno vasco actual lo aprobaron ustedes y rigor y seriedad

el rigor y la seriedad presupuestaria que ustedes defienden porque parece increíble que fuéramos a oír al pp decir que hay que endeudarse para financiar algo que no es inversión

era hasta ahora y pasar el marrón al gobierno siguiente o incumplir lo que ustedes mismos ustedes mismas establecen en los reales decretos legislativos